con ese diagnóstico político que no es el de artur mas y ni mucho menos el de la cultura política que él históricamente representa la del pactismo a toda costa

nosotras estamos de acuerdo con el diagnóstico político de ese cuarenta y ocho por ciento de esa mayoría social y política catalana

ninguno de sus méritos políticos ni mucho menos por eso no nos sorprende en absoluto señor urkullu que el presidente mas

porque él como usted sabe que es absolutamente imposible no hay cambio político posible del estado español desde dentro del mismo hay que salirse de él para obligarle a cambiar es el único modo de hacer que reconozca a las naciones vasca y catalana y que respete el proceso de autodeterminación de las mismas y los señores

porque piensan utilizar todo el peso de su ley para aplastar las exigencias democráticas

mayoritaria de los vascos y de las vascas en torno a cataluña se está cerrando en la actualidad un pacto de estado que no va a caducar el veinte de diciembre ellos

ciudadanos pretenden decidir el futuro político de cataluña al margen de lo que piense su ciudadanía legítimamente representada en sus instituciones

imponen una ley aprobada por la mayoría de la ciudadanía española para aplastar los derechos que democráticamente corresponden a los catalanes y a las catalanas utilizan

la soberanía catalana y reducirla a añicos así entienden estos la bilateralidad bitartean askatasunaren bidea

lurra inoiz ukitu gabe la postura de genuflexión resta perspectiva política porque desde ahí abajo se ve bien poco conviene tener siempre los pies en tierra pero con los pies es más que suficiente

un estado que nos quiere doblegados nos quiere sumisos no acepta que un pueblo una pequeña comunidad política de siete millónes de habitantes qué podemos decir de la nuestra de apenas tres pretenda decidir su propio futuro político para poder construir un país nuevo un país diferente

hay que decirle alto y claro que cuando una ley y su aplicación es injusta anteponer a ella los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas ya sean las vascas o las catalanas es una obligación ética para cualquiera que pretenda representar con dignidad a su pueblo en una institución

estaturik gabeko nazioen burujabetza ezeztatzeko erabili zuten recetas viejas en bocas de partidos tan nuevos espainiar estatua

maltrato sistemático a la sociedad vasca por parte del estado español

y además tienen la cara de acusarnos de insolidarios baina ez gaitezen engaina daukaguna defendatzeko ere modu eraginkor bakarra da

durante estos tres años largos se puede activar la mayoría parlamentaria que existe a favor del derecho a decidir del pueblo vasco venimos a decir que podemos utilizar los instrumentos que hoy tenemos a mano para hacer de ellos las herramientas que construirán el futuro de un país

un nuevo estado en europa venimos a decir que los y las veintiuno parlamentarias de eh bildu estamos dispuestas y preparadas para el debate para la negociación y para el acuerdo con el único objetivo de que los vascos y las vascas sean los únicos dueños del futuro de su pueblo

que estamos preparadas para la confrontación democrática con un estado que nos desprecia como pueblo pero que para ello necesitamos acuerdos entre vascos y vascas más allá incluso de estas cuatro paredes honakoa baldin bada

eskatzea asimismo porque también en términos de solidaridad hay que pasar de las palabras a los hechos aunque hoy no lo traigamos a votación

proponemos la creación de una comisión interinstitucional

compuesta de forma paritaria por representantes del parlament catalán y de este parlamento abriendo la posibilidad también a la participación del parlamento de navarra así lo decidiese es el momento de dar pasos es el momento de aprender

del proceso constituyente ajeno y de que el uno se puede apoyar en el otro y que ambos son necesarios para derribar esa puerta que cierra el camino

porque el objetivo del pueblo catalán y del pueblo vasco es el mismo

no consiguieron ponerse de acuerdo sobre la hoja de ruta sobre la vía a emprender hacia la soberanía quizás el cambio de interlocutores quizás aumentar

ayude en la creación de sinergias para abrir de par en par la puerta del estado español y que antes que tarde podamos hablar de un estado vasco y un estado catalán

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos buenos días señor

yo vengo a decir que es ciertamente complicado acumular tanta ignorancia democrática en apenas diez minutos de intervención

propone que este manifiesto o que este parlamento manifieste su reconocimiento y respeto al acuerdo democrático adoptado por el parlamento de cataluña el nueve de noviembre

nosotros venimos a decir que no es en absoluto un acuerdo democrático sino que es un acuerdo profundamente antidemocrático y por llamarlo de una forma clara es realmente un golpe de estado lo que se ha producido en cataluña eh bildu nos propone que este parlamento rechace

nosotros obviamente no la rechazamos la apoyamos eh bildu nos propone que este parlamento manifieste que el tribunal constitucional no tiene legitimidad para anular los acuerdos que adopte libremente las instituciones catalanas

y nosotros venimos a decir que tiene plena legitimidad y que además es su obligación con el objetivo de defender el interés general de los ciudadanos españoles

español a iniciar cuanto antes la negociación con el fin de facilitar el camino a un proceso consensuado de creación del estado catalán independiente en forma de república

de españa que impida este proceso y salvaguarde por lo tanto los derechos y las libertades del conjunto de los ciudadanos españoles eh bildu propone que este parlamento constituya una comisión para realizar el seguimiento del proceso de desconexión democrática

es profundamente antidemocrático y que por lo tanto votaremos en contra de todos estos disparates que nos ha propuesto hoy eh bildu demostrando ya digo sobre todo su profunda ignorancia de los procedimientos democráticos y de lo que es la propia democracia

ha defendido en esta cámara sabíamos que necesitaba clases urgentes de respeto a los más básicos derechos humanos hoy pidiendo con su camiseta la libertad de una delincuente nos lo ha vuelto

sabíamos también que necesitaba clases urgentes de democracia hoy el señor arraiz con su iniciativa y su intervención nos lo ha confirmado

más vale permanecer callado y que sospechen de tu necedad que hablar

nos ha demostrado que desconoce los más básicos principios democráticos algo interesante ha dicho el señor arraiz en su primera intervención aunque suene extraño el señor arraiz ha venido a decir que es el momento de aprender unos de otros bien nosotros gratuitamente le daremos al señor arraiz algunas clases básica de lo qué es la democracia sin ley

ez dago demokraziarik la ley y el cumplimiento de la ley son la base de la convivencia entre conciudadanos esto lo sabemos todos o lo deberíamos saber el señor arraiz lo desconoce en fin escuche

democracia el gobierno de cataluña debe cumplir la ley y el gobierno de españa debe cumplir la ley y hacer cumplir la ley y la constitución española también en cataluña al saltarse la legalidad vigente lo que han llevado a cabo en cataluña los enloquecidos dirigentes

es un golpe de estado y ante ese golpe de estado el gobierno de españa debe restablecer la democracia en cataluña a través de todos los procedimientos legales

incluyendo la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la constitución española que por cierto no tiene como objetivo la suspensión de la autonomía catalana en este caso sino el restablecimiento de los derechos de los catalanes vulnerados por sus propios dirigente enloquecidos el derecho a decidir tome nota señor arraiz tomen nota todos los diputados de eh bildu tomen nota también

ya existe y se ejerce en españa corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles quienes podemos y debemos y tenemos el derecho a decidir

el modelo territorial del estado o el futuro del país o la posible reforma y el contenido de la reforma de la propia constitución española lo debemos decidir

que ya existe y que nos asiste lo que los nacionalistas nacionalistas catalanes

pnv y eh bildu lo que los nacionalistas pretenden es justo lo contrario lo que pretenden es privar a una parte de la ciudadanía de su derecho a decidir

no puede obligarnos a asumir sus decisiones como ineludibles y obligatorias porque no lo son y tampoco puede tomar decisiones

porque no son de su competencia esto en fin no son opiniones de upyd

el sistema democrático sería interesante que el señor arraiz

al señor lehendakari sería interesante que escuchara estos conceptos porque en estos conceptos se basa la democracia y cuando uno desconoce estos conceptos se sitúa fuera de la democracia pero en fin nosotros insistiremos en algunos otros conceptos

atentamente porque esto es un debate político y es interesante escucharnos y también escuchar al que piensa de modo diferente la ciudadanía

la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles el derecho a la autodeterminación no existe en ninguna constitución democrática del mundo

es decir el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones

bajo ningún concepto una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del estado ni sobre cualquier otro aspecto o precepto de la constitución española excluyendo al resto de dicha eventual decisión y eso es lo que pretenden los enloquecidos dirigentes

como en las últimas semanas están haciendo un ridículo absolutamente espantoso ninguna autoridad o poder público tiene derecho

en su territorio de los derechos y libertades que la constitución española reconoce y garantiza a todos y cada uno de los ciudadanos españoles en fin

social y democrático y de derecho nadie está por encima de la ley y no puede permitirse trocear el cuerpo de la ciudadanía ni redefinir el sujeto de la soberanía nacional que no es otro que el conjunto de los ciudadanos españoles único que puede ejercer por los cauces

el derecho a decidir sobre la unidad del país y los derechos del conjunto de los ciudadanos como digo esto no son opiniones de un partido político

en los que se basa cualquier sistema democrático y en concreto nuestro sistema democrático alguno vendrá a decir

que en cataluña existe un problema político que hay que resolver

en cataluña existen muchos problemas políticos y sociales que hay que resolver entre ellos la corrupción política

el tres por ciento y las comisiones ilegales el paro el empleo precario el incremento de la pobreza el incremento de la desigualdad

los recortes sociales la sociedad fraccionada y enfrentada a consecuencia de los desvaríos nacionalistas o la existencia en cataluña de unos medios públicos de comunicación

al servicio del gobierno nacionalista de cataluña estos son los problemas que hay que resolver efectivamente en cataluña

e incapaces han sido efectivamente incapaces de resolver durante los últimos tiempos no resuelven ni uno solo de los problemas

que tienen los ciudadanos de a pie de cataluña y lo que hacen es añadir problemas nuevos romper la sociedad en dos enfrentar

en cataluña por lo tanto estos son realmente los problemas políticos que existen en cataluña y que hay que resolver en fin

además el gobierno de cataluña pretende romper el país con una representación en el parlamento de cataluña que no serviría ni siquiera para modificar el estatuto de cataluña su propuesta no solo es profundamente antidemocrática y claramente ilegal sino absurda en el mundo globalizado

y en la europa de ciudadanos que queremos construir en todo caso a día de hoy lo más importante es cumplir y hacer cumplir la ley en cataluña

y cada uno de los parlamentarios del partido nacionalista vasco porque luego se votará algo es si efectivamente el partido nacionalista vasco está de acuerdo con que se cumpla la ley

o no en definitiva si el partido nacionalista vasco hoy también va a apoyar a los golpistas en cataluña eskerrik asko maneiro jauna

eh bildu parece empeñado en convertir el parlamento vasco en una especie de sucursal del parlamento de cataluña

y de iniciativa propia para plantear asuntos que interesen de verdad a la ciudadanía vasca o bien porque el grupo proponente antepone sus obsesiones particulares legítimas pero particulares a los problemas que de verdad afectan a los vascos o quizá porque a lo mejor piensan ustedes que de esta forma ponen en aprietos al partido del gobierno cuestionando la solidez de sus convicciones abertzales e incitándoles a que hagan aquí barranquismo independentista como el señor mas

es que con iniciativas como esta solo consiguen lo primero retratarse en su monotema y evidenciar que carecen de un proyecto de país de verdad

y no nos parece a los socialistas que con mociones como estas consigan ponerle en graves aprietos al partido nacionalista vasco viendo las caras de sus representantes aquí y la del lehendakari

más bien al contrario creo que les está haciendo usted un favor porque solo alguien muy empachado de ideología como ustedes puede pensar que lo que está sucediendo con el proceso secesionista en cataluña liderado por el president mas

para la mayoría de la sociedad vasca entiendo que a ustedes les motiva mucho esto del ondear de banderas esteladas y proclamas inflamadas

y la construcción en el aire de una república catalana y digo bien en el aire donde desaparezcan milagrosamente todos los problemas y reine la felicidad

los independentistas catalanes y usted mismo en esta tribuna porque

que lo que está sucediendo en cataluña es algo que resulta atractivo para la mayoría de los vascos un ejemplo que tengamos que seguir aquí en euskadi

pues señores de bildu no es ninguna sorpresa para ustedes no esperen que el partido socialista les vaya a acompañar ni lo más mínimo en esa especie de despeñadero de la ruptura social y del desgobierno absoluto la postura de los socialistas sobre el laberinto

es sobradamente conocida y se resume en la enmienda que proponemos y en ella se recoge un principio que es de sentido común la necesidad de que todas las instituciones

vigente la compartamos más o menos porque esta es la única vía para garantizar la seguridad jurídica de todos sus actos en un estado democrático salvo que ustedes

sino al desgobierno les guste o no estamos en un estado democrático con sus defectos con sus virtudes con sus achaques también pero no muy distinto de la del resto de países de la unión europea y le recuerdo señor arraiz

del nueve de noviembre es el mismo tribunal que dio amparo a bildu y permitió que se presentara a las elecciones del dos mil once y el mismo que meses después legalizó a sortu como partido político el mismo tribunal constitucional

porque en un estado democrático lo legítimo es lo que está dentro de la ley esto no es un estado que no lo sea que no sea democrático por lo tanto ese es un principio básico y nadie niega que los parlamentarios catalanes que aprobaron dicha declaración

por supuesto lo que se ha impugnado es que tengan la capacidad para iniciar un proceso de secesión de cataluña de forma unilateral y al margen de cualquier procedimiento legal

necesitan una mayoría de dos tercios para aprobar una reforma del estatuto de cataluña con mucho menos apoyo parece impensable que se pueda iniciar un proceso de secesión

enfrentar a la mitad de la sociedad catalana con la otra mitad y así no se construye precisamente una nación y voy a citar aquí algo que he citado en muchas ocasiones cuando hemos hablado de estos recurrentes temas una frase del escritor gallego suso de toro hablando de las naciones la nación

es un ágora pactada y si no hay pacto no hay nación y lo que se está haciendo en cataluña no es precisamente buscar el pacto

la ruptura interna dentro de cataluña y carecen de legitimidad para hacer lo que están haciendo de la misma forma que este parlamento aunque lo hiciéramos todos los parlamentarios juntos no podíamos declarar el ingreso de euskadi en la alianza bolivariana para los pueblos de américa verdad aunque lo hiciéramos todos por unanimidad los setenta y cinco parlamentarios invocando ese hiperdemocrático derecho a decidir

lo que sí podemos hacer desde esta cámara y es lo que proponemos en nuestra enmienda a los gobiernos de españa y de cataluña a que abran vías de diálogo normalizado para tratar de resolver

en esa comunidad y canalizar sus diferencias a través de cauces institucionales y ya sabemos que no es fácil que no es el mejor momento cuando tenemos dos gobiernos en funciones en el caso de cataluña además transcurridos dos meses desde los comicios autonómicos aún no se sabe si se va a lograr formar un gobierno

debido a esas exigencias o si vamos a tener nuevas elecciones autonómicas en cataluña

contradicción en la que están incurriendo los partidos independentistas constituyeron a toda velocidad el nuevo parlamento para decidir por mayoría sobre lo que no tienen capacidad alguna para decidir algo tan grave como crear en el aire un estado independiente porque sí y sin embargo esos mismos grupos son incapaces de ponerse de acuerdo en decidir algo para lo que sí tienen plenamente capacidad de decidir

el gobierno de cataluña malos mimbres para empezar ninguna aventura deben ser los misterios de ese misterioso derecho a decidir esa especie de conjuro que algunos invocan para decidir una sola cosa de una vez y para siempre pero eso sí despreciando los procedimientos legales la transparencia y la igualdad de oportunidad en el debate público que no se está dando evidentemente en cataluña

planteamos en nuestra enmienda instar a los miembros del parlamento catalán a que encaucen la demanda de la sociedad catalana de reforzar su autogobierno mediante una propuesta

sin desplantes a la legalidad democrática ni saltos en el vacío y no es una invitación en el aire los socialistas tenemos una oferta concreta y viable probablemente la única

en el desarrollo del estado de las autonomías y se llama reforma de la constitución una reforma que hemos definido para blindar los derechos sociales

y también para dar respuesta a las cuestiones sobre las que estamos hablando

en los países de mayor éxito en el concierto mundial los que tienen una estructura federal reconociendo adecuadamente la pluralidad del estado no tenemos ningún problema

de naciones resolviendo los problemas de competencias y financiación detectados hasta ahora y creando los cauces precisos para que las comunidades autónomas puedan participar en la gobernanza común y desde luego como no vamos a ayudar a cataluña es con iniciativas como la que usted propone hoy con esa especie de estrambote de crear en esta cámara una comisión de seguimiento

porque además a ustedes les puede más las soflamas patrióticas de cataluña que saber

con los señoritos burgueses de cataluña implicados en la corrupción y parece que eso queda en segundo plano lo importante es romper el marco constitucional para qué no se sabe

como si ese hecho convirtiera a la sociedad catalana en el paradigma

y saben ustedes que eso ni es ni va a ser así eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

si hay alguna gestión avanzada que puede suponer incluso una especie de jurisprudencia política

problemas y conflictos que se están dando en nuestro mundo la experiencia de quebec y canadá desde luego apunta

marcar la prevalencia de la democracia tanto en su profundidad como en su extensión y se preguntan permanentemente cómo conciliar

principio democrático principio de legalidad cómo pueden actuar en simbiosis

esas dos fuentes de legitimación y yo creo que hemos tenido por parte de los comparecientes y yo creo que también en esta cámara

tener que concluir que hay que negociar que hay que dialogar y que hay que negociar pero evidentemente la legalidad no puede ser obstáculo no puede ser prohibición sino garantía

y está en la configuración de los sujetos o no si el pueblo catalán constituye un sujeto político sí o no porque después aplicar el procedimiento para decir no no

huir del problema enquistarlo convertirlo en conflicto eso hay que resolver por vías democráticas y evidentemente el valor prevalente de lo que libre y democráticamente la ciudadanía catalana o la vasca pueda decidir de ahí tiene que surgir una obligación

y eso es lo que permanentemente está intentando hacer el parlamento de cataluña

de esa vamos a decir triple idea de voluntad popular por un lado legalidad

y en tercer lugar iniciativas políticas la legitimidad de esas iniciativas políticas es lo que necesita una solución

la política es la encargada de armonizar eso tiene que ser la encargada de armonizar lo que puede ser una voluntad popular una opinión pública el principio de legalidad y también la legitimidad de las iniciativas políticas

cuando vemos que el estado se sitúa en la trinchera de la legalidad dice eso no es posible eso no existe porque no aparece en la constitución solamente existe lo que aparece en la constitución

determinadas leyes que regulan las relaciones entre personas hasta hace bien poco no existían esas leyes y no existían problemáticas sí o sea la ley tiene que atender a esa voluntad

es el reto de la política horregatik gure

egun on guztioi señor lehendakari egun on les tengo que confesar que hace falta

esta institución respetar mucho a este parlamento para venir a debatir con serenidad y entrar al trapo de este debate que se reproduce

esa noria que se mueve pero que no avanza que se mueve como ficción de avance

perder el tiempo en esta cámara para debatir sobre lo mismo

los mismos argumentos y para debatir además sobre cuestiones que objetivamente independientemente de las posiciones políticas que uno pueda tener de fondo para debatir sobre aspectos que son un esperpento político

que lo que está sucediendo en cataluña en cualquier caso tenga uno la posición que tenga de fondo política es un esperpento

cada vez más en la propia cataluña que podía estar incluso estar a favor de un proceso de independencia que podía estar a favor incluso

a la que se ha asumido a cataluña y con ella a los ciudadanos y ciudadanas de cataluña

la realidad la terca realidad es que tenemos que volver a debatir en esta cámara fundamentalmente

en dos posiciones claras que se concretan en lo que manifestamos en esta tribuna unos y otros pero que se concreta también en lo que ponemos negro sobre blanco

en los documentos que hemos presentado y de esta manera tenemos dos posiciones claramente diferenciadas por un lado quienes quieren que este parlamento

el proceso político iniciado en el parlamento de cataluña el partido nacionalista vasco quiere ustedes el grupo parlamentario que le sustenta señor lehendakari

y respetemos lo que está sucediendo en cataluña y por otro lado quienes reconocen y respetan el acuerdo democrático iniciado por

iniciado por el parlamento de cataluña y esta iniciativa es la de bildu eso es un bloque a quienes les parece bien lo que está pasando en cataluña y quieren que hoy lo respetemos y lo apoyemos partido nacionalista vasco y bildu y quienes creemos el resto de formaciones de esta cámara representados en esta cámara que es un esperpento

es lo más importante de todo pero

lo que está sucediendo en cataluña no es merecedor ni de reconocimiento ni de respeto lo que está sucediendo en cataluña lo que está sucediendo en cataluña por parte de unos político irresponsables

de rechazo y desde luego de confrontación política los políticos nacionalistas en cataluña en su camino hacia ningún lado

en una inestabilidad de incierto recorrido el desconcierto y tensión social que han provocado el abandono de cualquier vocación de gobierno

juegos de poder como estamos viendo estos últimos días el consiguiente abandono de los ciudadanos entre los que cunde una creciente preocupación

no se puede celebrar y no se puede ni se debe reconocer en cataluña los nacionalistas no entienden la política como la representación de todos los ciudadanos entienden la política como la representación de una parte de los ciudadanos y desde las últimas elecciones autonómicas sabemos que solo les importa el cuarenta y ocho por ciento de los catalanes

tienen unos dirigentes políticos que anteponen un supuesto derecho a romper la convivencia un país y su estabilidad económica a toda costa

en cataluña los dirigentes políticos no solo son políticos nefastos sino que además llaman a romper los marcos de convivencia lideran

culpan a los demás de sus desvaríos y sus desastres y eso no se puede celebrar ni se puede

en cataluña convergencia o como se vaya a llamar a partir de ahora esquerra republicana perjudican el progreso de cataluña y la inversión en cataluña y están provocando un menoscabo importante y preocupante en la economía

el viaje unilateral hacia el precipicio del incumplimiento de las normas de convivencia no es merecedor ni de celebración ni de reconocimiento

nuestra censura y el rechazo político más enérgico independientemente insisto de las posiciones que unos y otros puedan mantener sobre el fondo

no es merecedor de respeto ni es un mensaje edificante ni es una imagen edificante de la política y de los políticos y ya sé que esto que voy a decir ahora no importa nada no les importa nada

y probablemente a una buena parte del grupo parlamentario del partido nacionalista vasco pero aunque a veces parezca que estamos en clases de derecho constitucional y en clases de derecho prepolítico si es que esto existe lo que es una realidad es que el estado de derecho fue una conquista de los ciudadanos

para garantizar sus libertades y derechos frente a sus gobernantes

porque el estado de derecho consagra que nadie que nadie tampoco los gobernantes están por encima de la ley

principio fundamental del derecho occidental más básico

el parlamento de cataluña ha aprobado una resolución radicalmente inconstitucional que se impone unilateralmente y que prescinde de cualquier respeto

pero esto ya sé que les importa poco pero que se impone y que pretende prescindir de los principios básicos del sistema democrático

de derecho y con menosprecio absoluto a los ciudadanos de cataluña que las últimas elecciones en las últimas elecciones autonómicas votaron mayoritariamente para que esto no se produjera mayoritariamente

no se produjera y quienes hoy lideran este proceso han dado la espalda a la mayoría

quienes hoy han iniciado este proceso dan la espalda a la mayoría de los catalanes y lo primero que ustedes deberían de hacer por un mínimo de rigor

y no arrogarse la presentación de ningún pueblo porque empieza a molestar

cuando ustedes hablan y patrimonializan al pueblo vasco al pueblo catalán o cuando utilizan euskadi y cataluña como un todo patrimonializado y no es así

como cataluña no se pueden expresar ni se pueden definir con una frase

insisto en cataluña la mayoría de votantes rechazó en las últimas elecciones autonómicas

sucediera pero sorprendentemente y no sorprende la posición de bildu sorprendentemente el partido nacionalista vasco hoy en esta cámara nos pide esto que está sucediendo a través de su enmienda a la totalidad

porque no es insisto merecedor de respeto político no es merecedor de respaldo ni de celebración lo que está sucediendo hoy y además pretenden

a esta deriva nosotros creemos

no es el camino probablemente sea el camino a un precipicio sea el camino al desconcierto

al bloqueo al choque probablemente ese camino que han emprendido en cataluña lleve allí pero no es el camino desde luego a ningún sitio positivo a estos señores ese camino les interesa lo dicen lo reconocen y

les interesa el enfrentamiento el choque la bronca es un espacio cómodo es su espacio de confort pero ustedes ustedes de verdad

de verdad que creen ustedes que hay que reconocer lo que está sucediendo

así avanzamos pero hacia atrás volvemos a la construcción nacional para enmascarar la construcción social volvemos a los territorios y obviamos a las personas el desempleo los problemas de los jóvenes de las familias de los ciudadanos de los inmensos problemas

nadie se pronuncia en cataluña no es que no haya un gobierno hay un desgobierno absoluto con vocación de permanencia en el desgobierno porque ahora están en juegos de trileros

en la que están viendo a ver qué dice uno y qué hace el otro para ver si me apoya o apoya lo otro

no es un mensaje ni es un ejemplo edificante para nadie cataluña ha empeorado en los últimos años y eso no ha sido

ni el resto de españa lo que sucede en cataluña es única y exclusivamente responsabilidad de sus dirigentes hay muchas cosas que mejorar en el conjuntode españa sin duda

sin duda es un debate apasionante y necesario sin duda pero lo que no puede ser lo que no podemos aceptar como una verdad indiscutible dirigentes políticos que sumen a sus comunidades autónomas en el mayor de los caos nos culpen a los demás al resto de españoles y al resto de formaciones políticas de sus propios problemas en los que ellos mismos solos y sin que nadie les empuje se han metido porque esto comenzó con una reivindicación económica financiera

amaitzen joan y ha derivado y termino señora presidenta en el esperpento que todos estamos

y termino lamentando cuando los políticos en lugar de concordia

cuando en lugar de aportar soluciones a las personas

cuando en lugar de futuro se regodean en el pasado y lo peor de todo es que son las personas en este caso los catalanes todos los catalanes

los que van a pagar los desvaríos y la irresponsabilidad de sus dirigentes

no es un problema interno que tengan ellos y ellas su problema se llama el estado español no se llama españa siquiera se llama el estado español cómo entiende la democracia el estado español

surgió a partir de las necesidades cotidianas de los ciudadanos y las ciudadanas catalanas no

sino de problemas y de necesidades en el día a día y cómo el estado español

ha agraviado y ha insultado de forma cotidiana a los catalanes y a las catalanas no dando ninguna respuesta satisfactoria a sus necesidades y por contra creándoles nuevos problemas es por ello que muchos catalanes y catalanas que no han sido catalanistas nunca

son a día de hoy independentistas se sienten españoles son de cultura española

independentistas quieren un estado catalán donde las cosas se puedan hacer de una forma diferente no sabemos si mejor o peor

seguro que diferente ustedes hablan de legalidad y legitimidad y no entienden que estas confronten en el estado español es algo cotidiano

los derechos van por otro y nosotros y nosotras nos posicionamos a favor de los derechos por encima de lo que digan algunas leyes que son obviamente injustas que son objetivamente injustas sobre todo las que hablan de los derechos democráticos de los derechos básicos de los derechos civiles y políticos de los vascos y de las vascas

que allí ruptura interna poca poca

el nivel de diálogo político es bastante superior

y realmente la convivencia no está ni mucho menos fracturada en cataluña ni mucho menos y todos y todas saben que el problema estén en un lado o en otro en ese debate está con el estado español y con la actitud que tiene el estado español

pues podríamos hablar de lo que costó conformar el gobierno de andalucía susana díaz que costó bastante más y parece que por otro tipo de cuestiones y cuando hablan ustedes de la nación de naciones

nosotros y nosotras no somos españoles ni queremos serlo ni queremos serlo y queremos

de poder decidirlo y de poder vivir conforme a ello y si ustedes quieren seguir españoles tienen todo el derecho a hacerlo y nosotros y nosotras se lo vamos a permitir respetar y garantizar aunque vivan ustedes

y eso es lo que les diferencia a ustedes de nosotros por hablar de cuando hablaban ustedes de quién se coaliga con los burgueses y quién no quisiera recordar los presupuestos que acaban ustedes de aprobar

con un factor de corrección eso sí del cero coma treinta y dos por ciento ahí está ahí está el factor social que ustedes imprimen

alianza que ustedes tienen a día de hoy con un partido cuando critican

con convergencia y por último también decirles que no tengan ningún problema no tengan ningún tipo de inquietud que tenemos toda la confianza

tenemos toda la confianza y toda la seguridad de que en cataluña las fuerzas políticas a favor del cambio político a favor de la independencia van a tener el talento el ingenio y la creatividad necesaria para crear un gobierno que lleve hasta el último

este proceso a favor de la independencia eta gero

yo creo que este tipo de debates pueden servir para tratar de hacer pedagogía democrática y creo que todos los debates son interesantes ya sabemos que

nunca responde al resto de grupos y ni siquiera toma apuntes mientras intervenimos porque ya sabemos o ya sabe él lo que va a decir exactamente pero

y aprovechemos nuestras intervenciones para desmontar las mentiras del nacionalismo y defender determinados principios que son profundamente democráticos que no son de un partido político concreto sino que son la propia base de la democracia y es lo que he hecho yo en mi primera intervención

y se haya negado a responder nada de lo que un servidor ha dicho como habitualmente realiza pero creo que es interesante señalar que la ley tiene que cumplirse

la ley puede cambiarse evidentemente pero a través de los procedimientos legales establecidos y a través de las mayorías necesarias para hacerlo y que lo que está sucediendo en cataluña es de una gravedad extraordinaria y es ciertamente lamentable que hoy el lehendakari vaya a apoyar

esto es lo más grave del debate de hoy que el lehendakari que es el lehendakari de todos los vascos supuestamente vaya a decir que está de acuerdo con el esperpento catalán vaya a votar a favor de ese golpe de estado producido en cataluña porque aquí

digamos que aboga por otras vías aboga por otros procedimientos no termina de presentar su propuesta concreta pero aplaude el esperpento y la vergüenza que está ocurriendo en cataluña y ciertamente a mí me avergüenza tener un lehendakari que apoya lo que está ocurriendo en cataluña que

catalana un gobierno en cataluña que no resuelve ni uno solo de los problemas fundamentales de los catalanes y que además en fin lo que hace es añadir nuevos problemas y romper la propia sociedad huyendo seguramente

y que usted señor lehendakari vaya a votar a favor de ese proceso es de una gravedad extraordinaria venía a decir nuevamente

que en cataluña existe un problema político y que la legalidad

para que avance la voluntad de los ciudadanos pero hay que tener en cuenta cuál es esa voluntad si es mayoritaria o no

realmente a lo que exige una mayoría en este caso de ciudadanos españoles para impulsar las reformas que pretenden los dirigentes de cataluña y yo le quiero decir señor egibar que efectivamente la

no es ninguna trinchera en un estado democrático la ley no puede ser una trinchera la ley puede cambiarse pero tiene que cambiarse a través de los procedimientos legales establecidos esto no creo que sea muy difícil de entender nosotros también queremos cambiar la constitución española hay otros partidos políticos que también quieren cambiar la constitución española cada uno tiene sus propuestas perfectamente legítimas y democráticas lo que se tiene que conseguir es una mayoría en el congreso de los diputados para avanzar y producirse esos cambios pero eso no es lo que está ocurriendo en cataluña lo que está ocurriendo en cataluña es un proceso antidemocrático es un golpe de estado y ciertamente es triste señor lehendakari que usted apoye todo esto

decirle al gobierno de españa qué es lo que pensamos que debería hacer lo primero que hay que decir al gobierno de españa es que tiene que cumplir y hacer cumplir la ley y la constitución española en cataluña

es que aplique ponga en marcha la vía penal contra determinados dirigentes en cataluña por la comisión de delitos flagrantes tipificados perfectamente en el código penal

defender los derechos y las libertades de los propios ciudadanos de cataluña y lo siguiente y último que hay que decirle al gobierno de españa es que de financiar la independencia en cataluña es decir que no permita que los fondos que traslada el gobierno de españa a los dirigentes de cataluña sean dedicados para financiar la independencia algo que ha venido ocurriendo en los últimos años

por upyd el problema en españa son los nacionalismos periféricos que quieren romper el país y que quieren romper la convivencia pero

que han venido cediendo permanentemente ante los chantajes de los nacionalistas y es buen momento también este para recordárselo para recordar al pp

dar la razón y de ceder ante los desvaríos nacionalistas que se enfrenten claramente a sus mentiras que defiendan la unidad del país

del conjunto de los ciudadanos esto es lo que yo creo que tiene que decirse en un debate como hoy

en una pérdida de tiempo aún sabiendo de que efectivamente nacionalistas de un lado y de otro siguen en su noria dando vueltas a lo mismo y defendiendo

que usted salga aquí y acuse a los socialistas de que por treinta y cinco millónes hemos pactado los presupuestos quiero recordarle que usted aquí

gratis al gobierno vasco apoyar los presupuestos si iniciaban el camino a la independencia gratis

perfectamente como retrata a los independentistas catalanes las patrias por encima de las ideologías las banderas por encima de las personas

que nos quieren hacer creer a los demás que con un estado vasco o un estado catalán

ya no habría problemas sociales ni económicos ni laborales ni de gestión todo se solucionaría y saben ustedes que eso es falso

fue el señor mas quien cobraba tasas por dormir en un hospital público con un paciente fue el señor mas quien aplicó los recortes de los derechos sociales fue el señor mas y con ese mismo señor mas

porque la patria es más importante que las personas va a ser el que puede presumir

engañar a la ciudadanía eso no es de un izquierda laica como van ustedes

de la vieja escuela de cristianos renegados que es de lo que ustedes al final

porque no son coherentes porque no me querrán convencer ustedes de que un estado vasco puesto en marcha mañana mismo o dentro de un año soluciona los problemas de los ciudadanos vascos no es verdad

que pretendan hacer ustedes hacer comulgar a la ciudadanía con ruedas de molino ni en cataluña tampoco

con algunos ciudadanos catalanes yo tengo mucha familia en cataluña de un lado y de otro y están teniendo serios problemas de convivencia

y los otros están entre enfadados cabreados y resignados pero eso no significa que no haya problemas de fractura social en cataluña claro que la hay claro que la hay

y tiene razón el señor egibar nosotros también lo décimos en nuestra enmienda hace falta diálogo porque nosotros seguimos defendiendo que el problema

que se llama señor mas y tiene un responsable político que se llama señor rajoy

prácticamente solución pero eso no quiere decir que después se lleguen a otras conclusiones

en lo que ustedes plantean ya sabemos que el pnv siempre tiende a situarse un poco por encima del bien y del mal

muy acostumbrados pero no nos parece coherente eso de afirmar que se apoya fraternalmente

porque en el fondo se comparte el objetivo para decir a continuación que euskadi y el pnv tienen su propio camino y no van a ir por ese lado porque aunque eso se quiera presentar así ese comportamiento no me parece que sea ni coherente ni bueno con la sociedad catalana a la que se dice respetar

y me dice que se quiere suicidar yo no le digo que respeto que se quite la vida pero que yo no sigo su ejemplo intento convencerle de que no se suicide

con la clientela electoral con el señor mas y también con bildu se plantea una posición pues eso de equidistancia no se sabe cómo no

empantanados con el plan ibarretxe y esa consulta que usted sigue defendiendo que algo habrán aprendido ustedes de aquella situación porque quiero recordarle lo que decía el señor mas y compañía cuando estábamos aquí empantanados en esa situación

pero que ellos tenían el suyo propio que era distinto que era el gradualismo el seny catalán

afortunadamente para nosotros para los vascos porque en el fondo la cuestión es que por muchos agravios que se quieran meter en el puchero

tratar de resolver los problemas de relación de sociedades plurales y complejas como es esta y como es la catalana por solamente la vía identitaria

y a la fractura social eskerrik asko pastor jauna

más que arrepentida por no haber influido en las esferas de poder del partido popular

el propio partido popular que determinadas actuaciones o negociaciones o pasos previas si se hubieran dado hubiera evitado

el denominado conflicto catalán tal y como se advierte ahora hay gente hay personas

que han dicho que el estado no puede llegar a esta situación

debe negociar pero sobre qué base entonces nosotros lo que afirmamos es quienes pedimos el reconocimiento efectivo del pueblo vasco

pedimos ese reconocimiento por lo demás la ecuación ya se la hace

dice derecho a decidir sí todos los españoles y te dice reforma la constitución nunca vas a tener mayoría

el procedimiento tiene que servir la legalidad tiene que servir para darle cauce a esa voluntad democrática

si no huelga decir que todas las vías están

qué es lo que incluso en los papeles de loyola intentamos trenzar determinadas formaciones políticas y no voy a decir aquello de que la paz tenía precio porque nos consideramos todos demócratas

darle cauce cómo canalizar cómo hacer efectivas las decisiones de la ciudadanía vasca y es lo que estamos diciendo en el texto por cierto un texto sino idéntico similar se aprobó el año pasado también en esta cámara el primer punto

todos los grupos parlamentarios tienen el texto de las distintas enmiendas pero

reconocer y respetar el proceso político y democrático iniciado por el parlamento de cataluña como expresión democrática de la voluntad mayoritaria del pueblo catalán con el objetivo de hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir de los ciudadanos y ciudadanas de cataluña para determinar su futuro político colectivo es un reconocimiento de esta cámara

y el segundo punto que empalma directamente con el principio democrático y esa jurisprudencia política

al conflicto con quebec que dice que la aplicación del principio democrático más básico conlleva a que las instituciones de cataluña

se entenderán comprometidas a garantizar un proceso de negociación pero no cualquier proceso de negociación y no es un matiz

de común acuerdo la voluntad democrática de la sociedad catalana esas son las fórmulas avanzadas de resolución de conflictos que se están aplicando en el mundo por qué no podemos mirar y aprender también de esas mismas fórmulas o experiencias

que la unilateralidad y la apuesta por un proyecto independentista no se convierta en un fetiche

que no que las trayectorias están definidas las conocemos todos y que no sea un ejercicio de escapismo no se sienten ustedes interpelados desde la perspectiva incluso abertzale después de tantas décadas

no se sienten interpelados para entenderse con alguien parece que los veintisiete hoy de esta bancada para pactar unos mínimos básicos

sobre la existencia del sujeto político su derecho a decidir el gradualismo o no no se sienten interpelados nosotros sí amaitzen joan

en relación con el señor pastor porque a veces hacemos apelaciones todos

apelaciones al diálogo y les puedo asegurar que quien vamos que yo defiendo el diálogo como una de las herramientas fundamentales de progreso y de entendimiento

no como una maniobra de escapismo o como una bomba de humo para tapar otras series de cosas el diálogo es importante faltaría más y claro lo que no yo entiendo que estamos en un momento preelectoral señor pastor y que usted tiene que repartir responsabilidades

plano de responsabilidad al señor mas y al señor rajoy

la posibilidad de dialogar que nunca se ha negado a dialogar lo que ha dicho es que se niega a ser colaborador necesario del incumplimiento de la ley

eso se le supone y parece razonable también

no puede hacer otra cosa salvo que decir que está dispuesto a hablar de todo menos de incumplir la ley

porque le presionan y porque le coaccionan porque si algo ha habido también por parte de los dirigentes políticos en cataluña ha sido una utilización ventajista y una utilización torticera de un momento extraordinariamente complicado como ha sido el de la crisis económica

ventajista y torticera que venía a decir que españa nos roba cómo se puede dialogar es verdaderamente difícil dialogar con aquellos que están permanentemente insultando para conseguir un objetivo político españa nos roba en un momento de crisis económica en la que había muchas familias

robaban al parecer con el tres por ciento ciu y los pujol eso si sabemos que han robado la cataluña productiva

son mensajes que se han venido lanzando estos últimos años que no parece señor pastor que ayuden que faciliten o que inviten en cualquier caso a un diálogo sereno y razonable

decía que lo que piden es pedimos el reconocimiento político perdón el reconocimiento como sujeto político del pueblo vasco

reconocido en un documento fundamental que le invito a que se relea que es el estatuto de autonomía del país vasco que reconoce al sujeto político de esta comunidad autónoma como es un sujeto político y se lo he dicho muchas ocasiones como es un sujeto político

como es un sujeto político san sebastián como lo es vitoria

cada uno es un sujeto político que tiene su ámbito su capacidad su marco de actuación política amparado por la ley y reconocido por la ley

igual a la que le otorgó el estatuto de autonomía euskadi por primera vez ha sido un sujeto político gracias

se niegan permanentemente a reconocer pero no se preocupe que aunque sea a veces aburrido señor maneiro porque entienda usted que uno tiene fuerza y tiene ganas pero le interesa mucho más otros debates

por cierto debates que creo que son para los que realmente nos pagan los ciudadanos

de los nuestros o de las obsesiones de los diferentes partidos políticos se lo recordaremos insistiremos y seguimos

de respeto y de reconocimiento a la expresión mayoritaria del pueblo catalán

a lo que está haciendo el señor mas y lo que están haciendo las fuerzas nacionalistas mire las últimas elecciones autonómicas en cataluña fueron planteadas por los independistas como un plebiscito

y llamaron a los ciudadanos y se presentaron las elecciones sin programa electoral con un único

de cataluña y la campaña estuvo además centrada

el cuarenta y ocho por ciento de los catalanes el cuarenta y ocho por ciento de los catalanes les dieron la razón les respaldaron en las urnas el cincuenta y dos por ciento les dijeron que no

quienes han tenido menor respaldo electoral en cataluña

están metiendo al conjunto de los catalanes en esta deriva ese es el modelo del partido nacionalista vasco eso es lo que ustedes están dispuestos a hacer aquí

para buscar pactar unos mínimos con bildu yo le digo una cosa y termino ya señora presidenta para cerrar este debate

y créame que se lo digo

lo peor para esta sociedad lo peor para euskadi sería que ustedes buscaran el acuerdo a cualquier precio

para construir el futuro de euskadi con estos señores lo mejor lo más oportuno

también con el partido socialista también con upyd y también con el partido popular esa búsqueda del entendimiento y de acuerdo es progreso esa búsqueda del entendimiento con el diferente

y eso si me lo permite yo creo que es la seña de identidad de esta tierra

y nunca ha prosperado desde el enfrentamiento entre formaciones políticas

gai zerrendako hirugarren puntua mozioa javier ruiz de arbulo

de este pleno el debate anterior yo hoy les voy a plantear una cuestión muy sencilla muy sencilla y muy importante

en el sector público y dependen prácticamente del gobierno vasco

y así es de escueto y de simple para que pueda suscitar los apoyos de todos los grupos el mensaje que hemos puesto en nuestra moción es decir que de inmediato

el gobierno vasco restablezca las aportaciones ya pactadas generadas y ganadas por los trabajadores públicos a sus planes de previsión social

sin hacer es una cuestión simple es una cuestión sencilla para la que hacen falta dos cuestiones solamente la primera que haya dinero y la segunda que exista voluntad para hacerlo dinero evidentemente hay estamos

estudio elaboración de enmiendas de los presupuestos generales de la comunidad para el ejercicio dos mil dieciséis y ahí hay cuantías suficientes para poder destinar la parte correspondiente a hacer ese ingreso a lo largo del año que viene en la moción dice que se haga de inmediato bueno de inmediato entendemos no que lo hagan antes de final de año

en el año dos mil dieciséis para hacerlo más sencillo para restablecer ese derecho de los trabajadores de forma inmediata a partir de enero

las iniciales del primer mes del ejercicio que vamos a empezar luego si dinero tenemos lo que nos hace falta es la voluntad política de hacerlo

me decía que había una imposibilidad legal por parte del gobierno para hacer esas aportaciones

no era cierto pero claro en los tiempos de la interpelación tampoco da tiempo a argumentar esa realidad y es una de las enmiendas la del grupo nacionalista vasco

vamos a cumplir con esta obligación vamos a instar al gobierno de la nación a que levante las trabas legales que tiene no existen trabas legales

no existen trabas legales a hacerlo porque yo recuerdo que cuando se negoció la ley trece barra dos mil trece de presupuestos generales para el dos mil catorce o que recoge las medidas de los presupuestos generales

un portavoz del partido nacionalista vasco salió corriendo dándose golpes en el pecho y diciendo que habían conseguido arrancar del gobierno de la nación la mayoría absoluta

que habían conseguido el permiso para volver a hacer las aportaciones a los planes de previsión social voluntaria de todos los funcionarios de la comunidad

con lo cual si ellos lo habían negociado y ellos lo habían conseguido no entiendo por qué ahora nos dicen que es que hay trabas legales trabas legales que no existen sí es cierto

que el texto que ustedes propusieron y que se aprobó y que está incluido

va apareciendo en todas las leyes de presupuestos generales de los ejercicios siguientes incluida la del dieciséis sí que dice que

las administraciones podrán hacer esas aportaciones cuando no aumenten la masa salarial

de los presupuestos generales bien ese real decreto ley veinte barra dos mil once de veintiocho de diciembre que preveía

así como retirar la paga extra de los funcionarios para ese ejercicio la de diciembre de ese año ese mismo decreto ley tenía una serie de medidas entre ellas esta para efectivamente adelgazar el capítulo

en muchas administraciones muchos partidos muchos grupos políticos muchos portavoces criticaron esas medidas pero las adoptaron porque era obligatorio es decir se produjo el ahorro

en eso sí estamos de acuerdo nos ahorramos el dinero y lo dedicamos a otras fiestas pero luego décimos que es culpa del gobierno que nos ha obligado ya pero cuando se les abre la ventana y la posibilidad de volver a restituirlo entonces no hay impedimentos legales es curioso

a un recurso del abogado del estado ese miedo que no existe en otras ocasiones cuando realmente hay voluntad de hacer una cosa o de contravenir una disposición legal vigente ahí no importa que diga lo que quiera el abogado del estado porque hay una intención política

que tenía miedo a un recurso del abogado del estado y que por eso no habían introducido la medida en los distintos textos presupuestarios que se han aprobado en esta cámara a lo largo de la legislatura pues ese real decreto contenía otra serie de medidas

prohibiciones para contrataciones nuevas por parte de la administración pública y esas medidas esos deberes que han hecho todas las administraciones públicas resulta que

si es cierto que no ha decrecido su masa salarial no ha habido un aumento de los salarios de los funcionariosn hasta la previsión que tenemos para el dos mil dieciséis del uno por ciento

cuando ese artículo creo que es el tercero de ese real decreto veinte barra dos mil once dice que no se puede restituir que hay que ir amortizando las plazas de aquellos funcionarios que se jubilen que cuando los contratos de programa terminen no deben renovarse

vueltos a contratar en el gobierno vasco esa masa salarial

en los números de funcionarios que tiene el gobierno desde el año dos mil doce hasta ahora rondan entre los treinta y siete mil ochenta y tres el año que menos a los treinta y siete mil ochenta y ocho es decir aquí cuando se ha jubilado alguien o cuando ha fallecido por desgracia un funcionario

a los recursos de la abogacía del estado ahí no hay ninguna preocupación pero mientras tanto todo ese dinerito me lo voy guardando en el bolsillo y lo dedico a mis fiestas particulares o a los intereses verdaderamente políticos que tenemos en los presupuestos

la medida se puede tomar una de dos o ustedes negociaron mal en el año dos mil trece cuando exigieron al gobierno de españa que introdujera esa coletilla dentro de los presupuestos generales del estado y lo que hicieron fue

que sería una posibilidad o bien no tienen ninguna intención política de llevar a cabo esas aportaciones a partir de ahora el señor erkoreka recuerdo que me dijo en una ocasión en una comisión hablando de este tema que es que la comunidad de canarias no lo hacía y que la comunidad de baleares igual tampoco o castilla y león yo les vuelvo a

a mí me importa lo que ocurre aquí y resulta que dentro de nuestra administración pública vasca otros entes las diputaciones forales

sí están realizando las aportaciones por qué porque pueden hacerlas porque la ley se lo permite y yo no he visto cientos de recursos

por parte de la abogacía del estado diciendo ustedes no pueden hacer esto restituyan dejen de hacer esas aportaciones y soliciten la devolución de las indebidas no

al gobierno vasco yo sinceramente pienso que lo que no hay es una voluntad política el dinero lo tenemos la voluntad política nos falta

a la mesa general de negociación sinceramente yo no entiendo qué es lo que hay que llevar a la mesa general de negociación el reconocimiento de un derecho el derecho está ganado el derecho está reconocido qué hay que negociar con los representantes de los trabajadores cuándo lo abonamos cuando el gobierno quiera ellos van a decir que no quieren cobrarlo no

catorce el quince el dieciséis todos los años que ese dinero se lo ha ahorrado el gobierno vasco pero no valen esas declaraciones como nos hicieron aquí el otro día sobre la famosa paga extra del dos mil doce sí sí sí exigimos a que se abone de inmediato y el resto que se abone en el ejercicio dos mil dieciséis

en ese acuerdo presupuestario tan cacareado entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista siese abono que ustedes hicieron y votaron aquí

se ha reflejado en esos presupuestos ojalá que sí a mí me encantaría

ustedes la verdad en su mano han votado una cosa en el parlamento y la han reflejado en los presupuestos y los funcionarios de esta

van a recuperar tantola paga extra el restante como las aportaciones

social voluntaria no entiendo qué hay que negociar con los representantes de los trabajadores cuando la ley lo admite y cuando el resto de las administraciones vascas lo están haciendo yo creo que el problema es de voluntad que es muy fácil criticar el recorte cuando lo hace el gobierno de madrid es muy sencillo y aquí salieron todos en tromba la que se lio recortes que eran necesarios no vamos a entrar por qué eran necesarios los recortes no vamos a hablar del agujero descomunal que dejaron ustedes en la administración y por qué hubo que aplicar esos recortes que luego los han aplicado todos encantados de la vida

después aplican el recorte y luego le echan la culpa al tercero ajeno se ha bajado la masa salarial en la comunidad autónoma en la administración general se ha bajado no lo sé eso nos lo tendría que decir el lehendakari pero el otro día no quiso subir a contestar simplemente dice que hay cortapisas legales en madrid no no las hay la ley

cuando ustedes han gobernado y han tenido voluntad política para hacerlo

en el ayuntamiento de bilbao lo han hecho en los cientos de ayuntamientos que ustedes gobiernan en todo el territorio de la comunidad lo han hecho ahí no hay ningún problema legal

cuando lo ha hecho eh bildu en gipuzkoa en sus ayuntamientos en todos los ayuntamientos que gobiernan en la comunidad no había ningún problema

cuando el partido popular en aquellos lugares donde ha gobernado lo ha hecho tampoco había ningún problema y la delegación del gobierno no ha dicho nada no ha planteado ningún

coloque esto en la ley de los presupuestos generales del estado que nos permita poner en marcha las epsv de los funcionarios pero llega el momento de hacer los presupuestos

y son muchos millónes de euros los que hay que dedicar a eso no vamos a pensar en lo que se debe de los ejercicios anteriores olvidemos ese capítulo pero empecemos a pensar en el dos mil dieciséis tienen voluntad de hacerlo voten sí que hoy les pongo en marcha no tienen esa voluntad dedíquense a criticar los recortes a contar mil historias mil milongas y después en los presupuestos generales los aprueban y dicen no a las decenas de miles de funcionarios que están esperando

que no hay que negociar con nadie muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal sozialistak

de nuevo los socialistas queremos hoy defender la negociación con los representantes de los trabajadores como elemento nuclear de las condiciones en las que se garantizan sus derechos refiriéndonos hoy a la reanudación de aportaciones a realizar por parte del gobierno vasco a los sistemas de previsión social voluntario también hoy

en el pleno del veintinueve de octubre pasado sobre la forma de restituir una paga extraordinaria que fue injustamente retirada y que tratamos ese día en el pleno

a presentarse como un bombero pirómano quiere que arreglen

los problemas que él crea es quien por vía del real decreto prohíbe las aportaciones a las entidades de previsión social y quien pide hoy que se repongan quien ha impuesto las restricciones como solo el pp sabe con una mayoría absoluta que desoye a los ciudadanos pretende erigirse a un mes de las elecciones

podríamos llamarlo postureo pero visto el daño que ha causado este gobierno

porque este recorte adicional a otros lo generaron ellos como la supresión del abono de la paga extra de diciembre del dos mil doce además de reducir el número de días de permiso concedidos al colectivo entre otros recortes no les importó cargar nuevos recortes sobre el colectivo de funcionarios y además ha mantenido congelados sus salarios durante estos últimos cuatro años podía no haberlo hecho

ha sido un colectivo el de los funcionarios altamente castigado por los recortes del gobierno de rajoy ustedes podían haber adoptado otras medidas dirigidas a otros colectivos

pero no lo hicieron pero ahora como están las elecciones encima a pesar de que el recorte de este derecho lo han generado ustedes quieren venir aquí a lavar la cara y exigir al gobierno vasco que reanude el abono de las aportaciones la verdad es que ustedes prohibieron seguir realizando esas aportaciones desde el año dos mil doce

pero cuando le pide explicaciones la amama el niño no ha hecho nada la culpa siempre la tiene otro pues no seamos serios

en un parlamento y asuman la responsabilidad de sus acciones y sus recortes además poco han hecho para cambiar la prohibición a nivel nacional

lo único que han cambiado a finales del año dos mil trece en el momento de aprobar los presupuestos generales del estado es que aceptaron solo una enmienda en parte del gobierno nacionalista vasco

admitiendo desde entonces que se podrán hacer aportaciones siempre que esas aportaciones no supongan un incremento de la masa salarial en el caso del gobierno vasco el consejero de administración pública y justicia el señor erkoreka señaló en el pleno del veintinueve de diciembre de este año que esas aportaciones suponían un incremento de la masa salarial en nuestra comunidad autónoma

el problema es que no se ha elaborado ningún informe donde se demuestre que esa afirmación efectivamente es así esa es la duda que se plantea mi grupo parlamentario como también la tienen los sindicatos

a los trabajadores y trabajadoras afectados por los diferentes recortes del gobierno de rajoy y sentarse en la mesa general de negociación colectiva porque sí es necesario sentarse para volver a reanudar las aportaciones del gobierno vasco al sistema de previsión social y saber realmente

o existe un margen para poder realizar esas aportaciones la gran mayoría de las administraciones afectadas por la prohibición ya han hecho esas aportaciones

no lo ha hecho todavía el gobierno vasco todas estas administraciones tenían una intención clara

de nuevo y cuanto antes esas aportaciones aquí no es cierto que la ley de presupuestos lo condiciona a que no haya un incremento de la masa salarial pero para seguir defendiendo esa postura el gobierno vasco debería de demostrar que esa situación es realmente así y no lo ha hecho por eso creemos mi grupo parlamentario el grupo socialistas vascos creemos que se debe elaborar un informe en el que se demuestre que efectivamente esa situación es así

trasladarlo a la representación social no nos pueden pedir un acto de fe si verdaderamente tienen intención de reanudar esas aportaciones voluntarias elaboren ese informe que quede demostrado si efectivamente

o no por otro lado el partido popular viene aquí a exigir que se reanude la aportación

la redacción que para el año dos mil dieciséis recoge en la ley de presupuestos generales del estado y que se mantiene exactamente igual desde finales del año dos mil trece

por qué no han modificado la redacción donde se recoge dicha prohibición tal cual quedó redactada esa modificación a finales del año dos mil trece porque si la ley existe

ustedes han tenido la mayoría en madrid para hacerlo pero no lo han hecho

vienen aquí a exigir que se reanuden esas aportaciones sin cambiar nada la redacción existente qué ironía eso solo demuestra una vez más

de octubre de este año cuando se debatió sobre el abono de las cantidades todavía adeudadas a los funcionarios de la paga extraordinaria de diciembre del dos mil doce

que están presentando estas iniciativas exclusivamente con fines electorales y ganar así unos cuantos votos de los funcionarios

ver a los ciudadanos que se puede empezar a pagar ya porque la situación es mejor porque están en elecciones generales encima

por tontos y no lo somos han mantenido sus recortes sin importarles lo más mínimo durante cuatro años

y ahora vienen en puertas de las próximas elecciones que se celebran el veinte de diciembre a presentar iniciativas y decir que ya se puede empezar a hacer esas aportaciones

ya el pago del resto de la paga extra pendiente del año dos mil doce y ustedes han devuelto también los días de permiso que quitaron

que toda la situación generada por sus recortes porque son

hay que negociarla con los sindicatos es decir con la representación de los trabajadores afectados por los mismos porque tiene una gran importancia la situación que se ha creado y esa es la línea que se aprobó el veintinueve de octubre

de la paga extra del dos mil doce y en esta línea queremos seguir insistiendo en este pleno es vital

se negocien con los representantes de los trabajadores afectados porque la situación creada por unos y otros recortes es compleja y su solución en ningún caso puede ser impuesta por el gobierno al personal afectado

a informar de una decisión tomada ya de antemano por el gobierno vasco como se realizó respecto del abono de las cantidades adeudadas todavía respecto de la paga extraordinaria de diciembre del dos mil doce igual que tampoco puede decidir por sí mismo qué hacer

en qué situación se está y si hay margen empezar a aplicarlo pero lo primero que tiene que decir es si efectivamente se están pasando de la masa salarial en cuyo caso tiene que cumplir lo que dice

o si hay margen para poder realizar esas aportaciones y termino con la misma frase que expresé en el pleno del día veintinueve de octubre lo que sí queremos los socialistas vascos es que aprendan a sentarse en una mesa de diálogo social con quienes representan los intereses de esos empleados para acordar con ellos

todo lo que se ha ido dejando en esta crisis por eso sigo defendiendo

veníamos de un debate con un alto contenido político

contenido político y mucho contenido electoral sobre todo

porque a la hora de preparar este debate señor ruiz de arbulo

me han ido surgiendo unas dudas respecto a su forma y su contenido

en aspectos formales podría serme útil incluir un resumen de las diferentes disposiciones legales emitidas entorno a este tema durante los últimos cinco años el último lustro repasar las múltiples sentencias que se han venido dictando las diversas intervenciones

y en última instancia también las medidas efectivamente adoptadas en este último lustro por los diferentes órganos ejecutivos sitos

que llevo como parlamentario en esta cámara he de confesarle que he perdido mi inocencia al indagar sobre la cuestión que nos trae hoy aquí he descubierto aunque ya lo sospechaba que la clave de este debate no va por esos derroteros el pasado trece de noviembre

por los trágicos sucesos de esa misma noche en parís el señor ruiz de arbulo mientras dependía de las medidas recogidas en el real decreto ley

medidas drásticas que afectaron sobremanera a los empleados del sector público

decía ustedtextualmente se dejaron de hacer

a las entidades de previsión social voluntaria a muchos funcionarios se les obligó a trabajar más días porque había que aumentar la productividad

valientes y desagradables en un momento muy delicado que al partido popular le costaron

votos de los empleados públicos eso lo sabemos todos fin de la cita

señor ruiz de arbulo que en este resbalón mental radica la orquestación de esta iniciativa que procura ni más ni menos que recuperar esos votos perdidos tarea complicada por otra parte

viene desprovisto de la censura mental y revela

y evidente que en realidad usted piensa eso

vaya por delante que durante las últimas semanas he tenido ocasión de conocer al señor ruiz de arbulo

por sus habilidades parlamentarias y por su buen criterio jurídico ahora bien he de ser franco con usted

su aparente seguridad aplomo y vehemencia no se compadecen para nada con la verdad en esta ocasión está contradiciendo la verdad de forma intencionada y es por ello que a mi juicio su discurso argumentativo pierde

iniciativas cómo no pero partiendo de la responsabilidad política la pregunta es qué busca el partido popular con esta iniciativa

por contra qué ofrece hoy esta sesión plenaria

en este preciso momento ruido es esta una caja de resonancia magnífica y ustedes se ven en la tesitura cortoplacista de subir el volumen de aumentar los decibelios y así si la bronca fuera posible

sobre hojuelas tenía gracia oírle al señor sémper

hablando de la concordia y de venir aquí a aportar soluciones

pero a la hora de plantear este debate voy a hacer referencia

que había y hay legislación básica que condiciona el día a día de las administraciones públicas

entre otras las políticas de personal de las mismas no podemos olvidar que la estabilidad presupuestaria está consagrada constitucionalmente y que en abril del dos mil doce el gobierno

aprueba una ley ley orgánica para más señas llamada de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera pero yendo al tema que nos ocupa

prohíben expresamente a la administración de la comunidad autónoma hacer aportaciones a entidades de previsión social voluntaria de los empleados públicos es cierto que a partir del año dos mil catorce como consecuencia de una enmienda que presenta el grupo vasco en el congreso de los diputados como se ha dicho ese obstáculo se dulcifica cuando el gobierno popular

siempre que estas no supongan un incremento de la masa salarial pues bien vayamos a los textos legales

la ley de presupuestos generales del estado para el año dos mil dieciséis publicada muy recientemente el pasado treinta de octubre repite el esquema

y es literal en el año dos mil dieciséis las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior

en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación tanto por lo que respeta efectivos de personal como la antigüedad del mismo es decir

o este parlamento decide que las retribuciones del personal del sector público vasco se incrementa en un dos por ciento no podría hacerlo no podría hacerlo no en eso estamos de acuerdo ahora bien

durante el ejercicio dos mil dieciséis las administraciones entidades

a que se refiere el apartado uno de este artículo que incluye las administraciones de las comunidades autónomas y sus organismos dependientes no podrán realizar

colectivos que incluya la cobertura de la contingencia de jubilación

y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de la administración

las citadas administraciones entidades y sociedades podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo

siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al treinta y uno de diciembre de dos mil once eso dice la ley usted es jurista

es la que es y más cuando usted ha acudido a las comparecencias de diferentes consejeros

de forma repetitiva y reiterada he estado yo allí

a entidades de previsión social voluntaria y otras cuestiones relativas a la función pública como la cuestión de la paga extra suprimida de esas comparecencias

generales de la comunidad autónoma presentado por el gobierno vasco hace escasas semanas se extrae una conclusión la previsión de que el gasto

en un uno coma ocho por ciento con respecto a dos mil quince es un dato un dato no sujeto a interpretación usted sabe que al no existir en ejercicios anteriores consignación presupuestaria para las aportaciones a la epsv

en el caso de la administración de la comunidad autónoma un incremento de la masa salarial pero como tantos otros este no es un tema nuevo en esta cámara ni mucho menos este no es el debate pero no es un debate nuevo es un debate reiterado en diciembre del dos mil trece hace menos de dos años eh bildu tuvo a bien traer a debate las medidas que afectaban a los empleados públicos

la prohibiciones de las aportaciones a epsv etcétera en ese debate

defendía con uñas y dientes las medidas adoptadas por el gobierno del partido popular alabando el fundamento financiero en el régimen de gobernanza

aplicada a la función pública concretamente la señora llanos le espetaba a esto a la representante de bildu señora zulaika y cito lo que no vale es plantear medidas

de su modelo de financiación ya que ello responde a un modelo de hacer política demagógica facilona con escaso rigor y en última instancia hipócrita fin de la cita ironías del destino señor ruiz de arbulo

de contestarle en parecidos términos a los que hizo su compañera de partido

es que usted precisamente usted es el que tiene que hacer este papelón con esta iniciativa

por el grupo popular como son la seguridad jurídica

sí gracias presidenta entiendo que en este asunto digamos que hay dos

enfrentadas por un lado la defendida por el proponente de esta iniciativa y por otro lado el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco más allá de la posición digamos

socialista el grupo popular lo que nos propone y pide que

este gobierno vasco vuelva a hacer aportaciones a los fondos de epsv de los funcionarios aportaciones que quedaron prohibidas en dos mil once dentro del paquete de recortes que

aprobó para según se dijo en aquel momento evitar el rescate y asegurar la estabilidad presupuestaria el grupo

en la interpelación debatida en esta misma cámara hace dos semanas señalaba al portavoz del gobierno vasco que efectivamente las diputaciones forales y algunos ayuntamientos lo han podido hacer y no se han encontrado con recursos de la abogacía del estado porque según se decía

poder hacerlo y pedía al gobierno que busquen esa fórmula adecuada y procedan a hacer

básicamente lo que dice el grupo popular por lo tanto es que no hay obstáculos legales por lo tanto tenemos la posición del partido popular que viene a decir que efectivamente sí podemos o el gobierno vasco sí puede hacerlo

no no podemos porque nos lo impide la ley fue algo que explicó también hace dos semanas el portavoz del gobierno vasco y hoy aquí el señor

ya que la condición que impone es que la realización de esas aportaciones no suponga incremento de la masa salarial y el señor erkoreka decía que cuando las condiciones económicas

siempre y cuando se levante esta prohibición y acusaba al portavoz del grupo popular de electoralismo y le señalaba que

por el pp la prohibición es taxativa contundente no hay margen por lo tanto hay digamos dos posiciones una la defendida por el grupo popular que viene a decir que efectivamente sí se puede hacer la ley lo permite

que viene a decir no se puede porque la ley nos lo impide ciertamente llama la atención cómo el gobierno vasco y el partido nacionalista vasco recuerda cuál es la legalidad vigente

imposibilidad en este caso de aplicar determinadas medidas recurriendo por lo tanto a la normativa básica y a la legalidad española cuando en otras ocasiones lo que pretenden es vulnerar esa legalidad vigente en todo caso ya digo que

el grupo popular y viene diciendo es que sí se puede y que el partido nacionalista vasco lo que dice es que no se puede que la ley nos lo impide por otro lado es cierto

esta medida fue uno de los muchos recortes impulsados por el partido popular contra los funcionarios ahora pretende lavarse la cara y en época preelectoral propone esta iniciativa creo que en este punto básicamente estamos todos

posición de upyd para finalizar con mi intervención las aportaciones a los planes de previsión social voluntaria a los funcionarios no es una fórmula que nos guste demasiado

es ciertamente un sarcasmo que sea el pp quien presente ahora esta iniciativa pero entendemos que es un derecho adquirido de los empleados públicos y por lo tanto

que la ley lo permite por lo tanto votaremos a favor de esta iniciativa más allá de que sea defendida por el grupo popular porque consideramos que es justa y que la ley podría permitirlo en caso de que esta iniciativa no salga y supongo que no saldrá estaríamos dispuestos a votar a favor de la iniciativa

en relación a las aportaciones como se ha dicho ya en las anteriores intervenciones el decreto ley del dos mil once de treinta de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria tributaria y financiera para la corrección del déficit público impone importantes en las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores públicos entre ellos están las aportaciones de las administraciones

entidades de previsión social complementaria recortes que se aplicaron y se aplican

uno más un recorte más este del que estamos hablando hoy

recortes congelación salarial congelación plantillas tasas de reposición del diez por ciento aumento de la jornada laboral entre otros con la aprobación de la ley de

veintitrés de diciembre de presupuestos generales del estado para el año dos mil catorce se abre la puerta con unas condiciones para reactivar los planes de pensiones

gracias presidenta coinciden todos los representantes

yo he presentado esta iniciativa cuando he llegado a esta cámara pero es que yo entré en octubre formalmente entré en julio pero hasta que no había plenos no entré y en cuanto tuve oportunidad y vi los presupuestos lo planteé

pues planteé la interpelación el lehendakari qué se ha vuelto a marchar el otro día ni siquiera subió a tribuna a contestarme hoy se ha marchado en el debate esa es la preocupación que tiene por los funcionarios del gobierno vasco

en ese momento es cuando lo planteo a mí me da exactamente igual que haya elecciones

y usted viene aquí con su discurso escrito desde ayer o antes de ayer en casa viene lo lee y le da exactamente igual lo que yo le haya dicho antes

y usted tiene unos conocimientos jurídicos importantes y además usted es funcionaria y sabe que lo que ha dicho no es cierto mire usted esto no es electoralista yo antes de estar en esta cámara estaba en el gobierno foral en el año dos mil catorce

a hacer las aportaciones a los planes de previsión social voluntaria de los funcionarios cuando la ley nos lo permitió y cuando hicimos los ajustes necesarios en la masa salarial

los informes están hechos desde dos mil doce por elkarkidetza se pueden utilizar

lo sabe o al menos debería saberlo y señor latxaga no fue un lapsus mental hablar aquí de los votos que esas medidas costaron al partido popular en absoluto

una medida dura una medida valiente y por qué era valiente porque sabía que esa medida

le iba a costar muchos votos y cuando se han dado las condiciones hemos cambiado la legislación a instancias suyas para qué

que es lo que han hecho no me cuente nada de la masa salarial tomen las medidas oportunas se lo vuelvo a repetir diputación foral de álava la de gipuzkoa

están realizando las aportaciones eso no es electoralismo lo empezamos a hacer en el dos mil catorce y el otro día hablábamos de la paga extra

para introducir en los presupuestos de la comunidad del ejercicio dieciséis el setenta y cinco por ciento que falta de pagar no hay ninguna cortapisa legal está no por qué porque no interesa porque interesaba en su momento criticar al gobierno de rajoy que había tomado la medida pero cuando tiene la posibilidad de devolver el dinero no lo hacen

su argumento y usted también me cae muy bien le devuelvo el piropo de antes por supuesto

que si se lo lee bien le dice que no debe incrementarse la masa salarial

no la incrementen en otros conceptos que lo hacen otras instituciones se lo vuelvo a repetir pero fíjese cuando no conocían el texto definitivo de los presupuestos generales del estado es decir esa coletilla que decía que tiene o no tiene que incrementar la masa salarial pero sí estaban negociando en madrid introducir eso

dónde estaba no estaba luego si al principio de mi intervención les decía hace falta dinero

voluntad cero no estaba en el texto

pero vamos al año siguiente ya está aprobada la norma en madrid dónde están las medidas que se toman para hacer efectiva

voluntad cero vuelven a traer ley de presupuestos y no existe la partida es curioso y el resto de las instituciones

pero hicieron la modificación presupuestaria y lo pagaron no me cuente usted nada

sino simplemente cumplan la voluntad de este parlamento de terminar esos recortes que yo asumo que los hizo un gobierno del partido popular claro que lo asumo que no es ningún lapsus por supuesto que lo asumo

pero eran necesarias y las administraciones que hicieron caso de esas medidas pueden pagar la paga extra las aportaciones y otra serie de gastos qué ocurre que al hacer los presupuesto miramos para otro lado bueno ese es un problema suyo pero salga usted y cuénteselo a los funcionarios si no quiere no se lo cuente hoy

si yo sigo en esta cámara en enero y no han cumplido no se preocupe que volveré

no es una cuestión de crítica es muy sencillo quieren que se paguen las aportaciones a los funcionarios háganlo por cierto aparte de otras instituciones creo que esta propia casa también lo está haciendo y no he visto en ningún sitio la queja

ni la sentencia que le condene por incumplir ninguna legislación vigente muchas gracias